un país justo y solidario de hombres y mujeres libres

a las generaciones futuras en definitiva un pueblo de personas solidarias y libres porque solo siendo libres podremos aspirar a ser felices y a conquistar

saben ustedes que durante la campaña electoral antes de que la ciudadanía votara nosotros sí poniendo todas las cartas boca arriba ofrecimos al partido nacionalista vasco y a elkarrekin podemos

justicia social paz y convivencia y derecho democrático a decidir nuestro futuro ahora no ha podido ser

ekintzaile jeltzaleak artículos de amama liburuan dio los exiliados no son de ninguna parte

y cuando están en este quieren volver a la primera beraz nire gaurko lehenengo hitzak

también a las que adiario sufren miles de personas por su orientación sexual

presentaremos sendos proyectos de ley para garantizar de forma integral

y la diversidad sexual además de reconocer la autodeterminación de género esta actitud decidida en torno a la igualdad será de gran ayuda para avanzar también como sociedad para hacer un país desarrollado un país pacífico un país

eliminando desigualdades podremos continuar dando pasos para garantizar la necesaria solidaridad intergeneracional y comprender que los problemas de los demás

la ultraderecha puede llegar a la presidencia de la república en hungría gobierna ya

derecha autoritaria en españa pues ya hablaremos más

y europa claman algunos europa europa pero qué europa la europa que destila tintes xenófobos

al brexit y azuzando el voto al brexit la que ha condenado a generaciones de hombres y mujeres en grecia a la miseria

y millónes de euros a sus bancos como en españa la que pacta con turquía y cierra los ojos ante las violaciones de los derechos humanos

y los ciudadanos vascos vivan mejor vivan como se merecen y que entre todos seamos capaces de ir transformando social y económicamente esta sociedad para que alcancemos mayores cotas de bienestar

porque no tenemos en nuestra mano todos los instrumentos necesarios para avanzar no podemos legislar libremente

y el empuje de este pueblo choca una y otra vez con medidas que nos vienen impuestas que no hemos decidido aquí y creemos que hay que poner fin a esta situación

las administraciones pueden hacer mucho por el empleo desde luego mucho más de lo que hacen en europa cada cien personas que trabajan veintiuno lo hacen en el sector público si aquí llegáramos a ese nivel podríamos crear cuarenta mil nuevos puestos de trabajo en la administración pública

guardas forestales ingenieros electricistas administrativas podríamos poner por un ejemplo

habrá que incentivar la contratación en el sector privado pero con criterios de eficacia social la administración puede ayudar con dinero a las empresas privadas pero debe exigir garantías de que esas ayudas revierten en la sociedad pero ya digo que no solo es tener un empleo es además que te paguen dignamente por ello

mil doscientos euros al mes debería ser el salario mínimo mila berrehun euro hilean horixe da gure proposamena

eragin daiteke zuzenean ere ingurugiroaren zainketan debemos proteger especialmente a nuestra juventud y a las personas de más edad también pero ciertamente no podemos tener pensionistas que cobren cuatrocientos euros al mes

y ustedes saben perfectamente lo que cobra la compañía de luz al mes

el teléfono o lo que hay que pagar en la contribución o en la cuota de la escalera y además resulta que los pensionistas tienen que vestirse incluso tienen que comer

sumen y díganles luego que cuatrocientos euros tampoco está mal y que menos es nada eso debe acabar y se debe acabar ya

esa es la propuesta de euskal herria bildu una propuesta realizable y que afectaría unos ciento sesenta mil de nuestros compatriotas que son los que ahora mismo no llegan a esa cantidad

tenemos una sociedad que está a punto de ir a dos velocidades

y gente que vive con grandísimas dificultades y es muy fácil demasiado fácil pasar a tener dificultades de la noche a la mañana por algún imprevisto

sin absolutamente nada hablar de emergencia social no es una expresión alarmista es una realidad podemos cerrar los ojos y pensar que en otros sitios están peor

de forma que pueda llegar a todas las personas necesitadas dejando atrás los recortes de la administración del partido socialista que luego mantuvo la administración del partido nacionalista vasco

debe ser completada con la creación de la renta básica para la infancia y la adolescencia no podemos pretender contar con jóvenes emprendedores y preparados si han estado viviendo en la miseria durante la infancia

miles de cuidadoras y cuidadores que además en su inmensa mayoría son cuidadoras cuidadoras de niños y niñas de gente mayor de gente con problemas

la mayor recompensa es una sonrisa o un abrazo por parte de la persona a la que cuidan ese trabajo quizá el más digno de los trabajos y desde luego el más desinteresado merece y precisa un reconocimiento mayor

tarde o temprano todas y todos necesitaremos a alguien que nos cuide y nuestra administración

begiratu ezkero ehuneko lautik gora dago hainbat tokitan urge por tanto que como sociedad asumamos que es imprescindible investigar e innovar y que hay que dedicar recursos a ellos no es posible que durante los últimos cuatro años año tras año hayamos visto reducido el dinero que se dedica a investigación y desarrollo

nuestra política industrial debe primero cambiar de mentalidad luego plantearse ambiciosos retos de futuro

en los próximos veinte o treinta años si echamos la vista atrás veremos que también en esto nos parecemos cada vez más a españa y que en los años de crisis

y de negocio nuestras fábricas no pueden limitarse a hacer piezas diseñadas en el extranjero a buen precio

y tampoco queremos ser un país de servicios que no aporten valor por eso como decía antes es imprescindible invertir en investigación e innovación

loratu egiten delako investigación y desarrollo también en el área cultural la cultura es algo que nunca acertamos a definir

sin la cual ni tan siquiera estaríamos hoy aquí y debe desarrollarse en clima de auténtica libertad debe ser objeto de especial protección

los creadores los colectivos los pequeños grupos que están en nuestro país y que se juntan para crear un coro para representar una obra de teatro que salen a la plaza para trasmitir nuestros bailes escritores escritoras cantantes los veremos a muchos y muchos de la semana que viene la feria de durango actrices

se merece nuestra atención como lo merece toda la gente que es desde hace muchísimos años trabaja en favor del euskera

a las empresas que desarrollen planes de aprendizaje y utilización del euskera euskaldunek diskriminaziorik gabe bizitzeko eskubidea dute eta dugu eta hori

que se nos va el dinero por el fraude en las prestaciones sociales además de no ser cierto y a los datos me remito lo que hay detrás es ese runrún

que tiene una clara intención y la clara intención es que no se ponga el foco en el lugar si el pequeño defrauda el fraude es pequeño pero cuando lo hace el grande pues

creemos que es preciso crear el observatorio independiente del fraude fiscal

y para luchar contra el fraude para que proponga medidas y deberemos vigilar sobre todo el tipo del impuesto de sociedades sobre todo el que pagan o el que no pagan también las grandes empresas además

ezin dira parekatu ez delako gauza bera y les es debido también un exquisito respeto por todos los derechos humanos los de todas las personas

y encarar el futuro con esperanza por muchas cosas pero sobre todo porque se lo debemos a quienes han sufrido tanto euskal herriak

muchisimas referencias a reformas a cambios necesarios inversiones

aquí sin embargo no lo es siempre estamos mirando de reojo a españa

nos lo van a anular ya nos lo han recurrido ya nos lo han anulado creemos que ha llegado el momento de decir basta esan behar dugu ez dugula inoren uztarpean

de las personas que votaron en septiembre apoyó el derecho a decidir

suficientes insuficientes de falta de apoyo que otro apoyo que otra idea recibe mayor nivel de apoyo voy a tratar de decirlo muy claro para que todo el mundo me entienda el setenta y cinco por ciento de apoyo sea en este parlamento o en cualquier otro

es una mayoría tan amplia que nadie puede cuestionarla todo lo demás son excusas y no vamos a aceptar que en nombre de no se sabe muy bien qué transversalidad o mucho menos

hoy por hoy un gobierno presidido por euskal herria bildu es la garantía de poder avanzar en este camino desde este mismo momento baina lehen ere esan dut euskal herria

pues la restauración monárquica del setenta y cinco en españa tenía un vicio de origen

eligiendo además a alguien que no le tocaba saltándose incluso la propia legitimidad monárquica básicamente para que todo siguiera igual

luego se aprobó una constitución para darle a todo cierta apariencia democrática pero el vicio de origen persistía y persiste con formas más o menos homologables el núcleo central de defensa de la unidad

admiración tanto escocia como cataluña porque su ciudadanía ha sabido articularse de forma

cauce a una demanda absolutamente democrática y también porque sus instituciones han sabido estar a la altura de la ciudadanía asumiendo los liderazgos que les corresponde cada país escribe su historia euskal herria escribirá la suya pero no al dictado de nadie la ola por la libertad que recorre europa debe llegar y llegará también a nuestro país

una administración que se aprovecha de la ignorancia de los administrados o que juega con alargar plazos o dar un no por respuesta creyendo que el ciudadano no tendrá ni ganas ni dinero los tribunales no es la administración que queremos

han sido los que en años duros también para ellos porque les bajaron el sueldo de la noche a la mañana les quitaron una paga extra que están

aunque la bajada de sueldo sigue igual pues quiero mencionar a estos hombres y mujeres que con su trabajo diario han conseguido que este

mantuviera en gran medida sus avances decía que la

a sugerirnos a todos que también en esto desespañolicemos la forma de hacer política en euskal herria señora presidenta señoras y señores

porque creo firmemente que nuestro país necesita avanzar

otros cuatro años y vengo a pedir la confianza de esta cámara porque creo que este pueblo debe decirle al mundo entero alto y claro que aquí hay un país que quiere porque quiere vivir mejor euskal herria bildu es la única garantía de que eso pueda ser así y desde luego les aseguro que trabajaremos

comparezco con el objetivo de obtener su respaldo para ser lehendakari de euskadi lo hago consciente de la complejidad y dificultades de nuestro entorno comprometido con una euskadi que acierte a mantener el espíritu de acuerdo

para seguir avanzando y garantizar el futuro las elecciones del veinticinco de septiembre han vuelto a poner de manifiesto que euskadi es una sociedad diversa y plural

el resultado obtenido por la candidatura del partido nacionalista vasco que encabecé tiene plena legitimidad para plantear mi investidura pero es evidente que no es suficiente estas últimas semanas el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

a mi candidatura y plantear un programa de futuro el acuerdo alcanzado crea un núcleo que dota de estabilidad a la acción del gobierno aunque sin duda

para avanzar en la gobernabilidad de euskadi presentamos un programa para dar respuesta a los retos fundamentales de un país en crecimiento son los cuatro pilares de nuestro proyecto uno desarrollo humano

igualdad y servicios públicos de calidad dos empleo reactivación y sostenibilidad tres convivencia y derechos humanos

cuatro pilares que conforman la sólida base sobre la que seguir construyendo la estrategia de desarrollo humano y crecimiento sostenible de euskadi hacerlo además

y con más autogobierno afrontamos esta nueva etapa asumiendo los principios de realismo responsabilidad y sostenibilidad

e institucional nuestra prioridad sigue siendo garantizar el crecimiento y generar empleo esta es sin duda la mejor política social

mantenemos el compromiso demostrado con los servicios públicos esenciales como garantía de cohesión y calidad de vida

nos corresponde seguir tejiendo el encuentro social pasar de la coexistencia a la auténtica convivencia el autogobierno es el motor de la institucionalización de euskadi y explica los niveles de bienestar que hemos alcanzado

actualizar y seguir avanzando en el autogobierno vasco responder a estas prioridades demanda crear las condiciones de confianza y certidumbre que necesita nuestro país para ello planteamos un programa que se fundamenta en garantizar la estabilidad y gobernabilidad de las instituciones públicas agradezco al partido nacionalista vasco y al partido socialista

una visión de euskadi y de la acción que debe emprender el nuevo gobierno y cito en representación de todas las personas que han hecho posible este acuerdo

e idoia mendia eskerrik asko este acuerdo entronca con una historia de colaboración puesta en marcha con el primer gobierno vasco hace ahora ochenta años hoy presentamos un programa que entronca también con la colaboración mantenida esta pasada legislatura

un plan que ha funcionado y sigue dando frutos el partido socialista ha negociado y ha aprobado los presupuestos de nuestro gobierno estos tres últimos años pasados

destacando la puesta en marcha del instituto gogora y hoy es pertinente recordar que las últimas transferencias de autogobierno vasco se lograron con el último gobierno socialista del estado reeditamos este espíritu de colaboración

a todos los grupos vamos a mantener el diálogo político y buscar acuerdos que nos permitan avanzar y desarrollar euskadi tengo que reconocer que en el análisis comparado de los programas electorales de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria

esta intervención se orienta a fortalecer el espíritu de colaboración y acuerdo ofrecemos la mano tendida para avanzar desde el consenso

nuestra acción política de estos cuatro años se va a desarrollar en un entorno global de incertidumbre la realidad económica social y política es compleja europa se encuentra en el centro de esta nueva realidad la tensión en los países del este la guerra islámica de oriente medio el terrorismo internacional

están poniendo a prueba el espíritu de construcción europeo los próximos meses y años vamos a vivir momentos de inestabilidad y

nuestro proyecto de futuro para europa es el mismo que deseamos para euskadi una europa competitiva y justa que avance hacia un espacio de mayor integración política social

en este sentido quiero mostrar mi sintonía con las decisiones orientadas a poner en marcha una política económica que apueste por el crecimiento y la inversión en europa

y lo reafirmo debemos mantener el rigor económico y presupuestario ahora bien debemos apoyar el ciclo de crecimiento

a la inversión productiva este es el modelo de desarrollo en el que creemos políticas de estímulo inversión productiva y sensibilización social además coincido con la idea de que es necesario

estamos en un momento clave para redefinir el proyecto europeo

es fundamental para seguir avanzando desde un proyecto compartido la conmemoración del tratado de roma durante los próximos meses debería ser el momento para emprender un nuevo proyecto europeo del que euskadi quiere ser partícipe en cuanto al ámbito del estado

la conformación del nuevo gobierno español no ha despejado las dudas e incertidumbres la fragmentación política es una realidad en toda europa

pero la falta de diálogo y de entendimiento marca el futuro político de españa es necesario afrontar con determinación la actualización del modelo de estado asumiendo su carácter plurinacional es necesario apostar por un modelo social y económico

esta situación afecta a euskadi por ello planteamos que el estado avance por un camino en el que las naciones encontremos nuestro reconocimiento

edo dituen kudeaketa eredu bat desarrollo humano integración social igualdad y servicios públicos de calidad son la base firme sobre la que se asientan nuestro proyecto

el deber de la administración pública es garantizar la dignidad de las personas

la redistribución de la riqueza y la atención a las personas más desfavorecidas la cohesión y justicia social es componente irrenunciable para el futuro de euskadi

este es un convencimiento personal y político que forma parte de nuestro ideario estamos comprometidos con un país justo

euskadi se ha significado desde los años ochenta por desarrollar su propia agenda social para la integración y la igualdad hace veintisiete años fuimos la comunidad pionera en poner en marcha el ingreso mínimo de inserción estos últimos años

diría que del conjunto de las instituciones públicas vascas hemos vivido años de necesidades crecientes y recursos públicos muy limitados garantizar las políticas sociales ha sido la prioridad y va a seguir estando en el núcleo de la acción del nuevo gobierno este es un compromiso central de nuestro proyecto

vamos a favorecer la inclusión social garantizar unos servicios sociales accesibles y de calidad nuestro reto es compartido

reducir en un veinte por ciento la tasa de pobreza en euskadi las políticas sociales conforman el ámbito con mayor nivel de competencias compartidas

vamos a profundizar en la coordinación con diputaciones forales y ayuntamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de servicios sociales

regular y dotar de sostenibilidad a las prestaciones y servicios incluidos en el decreto de cartera de servicios sociales garantizar las ayudas de emergencia social desarrollar el derecho a la vivienda en los términos reconocidos por la ley aprobada en esta cámara también

una realidad que debemos seguir combatiendo salud y educación son dos servicios públicos básicos de la sociedad avanzada y de bienestar creemos en el derecho universal a la salud y apostamos por seguir mejorando paulatinamente

compromisos concretos despliegue del plan de cuidados paliativos

atención especial a las personas con problemas de adicciones incremento de la inversión en investigación e innovación sanitaria nuevas infraestructuras en eibar

es garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades esta es una prioridad de nuestro proyecto hemos logrado garantizar un nivel de calidad universal es evidente que nuestro próximo reto es seguir avanzando en la excelencia

un pacto educativo para una nueva ley vasca de educación un proyecto que va a necesitar amplios consensos con la comunidad educativa

más compromisos adoptados formación y estabilidad del profesorado inversión en nuevas infraestructuras educativas en basauri ugao güenes bilbao muskiz zabalgana errekabarri en gasteiz

impulso a la modernización tecnológica de la enseñanza reforzar la política de becas de la carrera investigadora

y nuevo plan de formación profesional defendemos también un desarrollo humano y cultural para la convivencia compartimos los siguientes compromisos impulsar una cultura integradora y abierta vamos a dar continuidad al programa kultura auzolanean

especialmente en su proyección exterior avanzar en una sociedad bilingüe en este sentido vamos a mantener la senda del consenso logrado por la agenda estratégica del euskera y desarrollar las propuestas del documento eta hemendik aurrera zer

vamos a fortalecer la colaboración con el gobierno de navarra y con la institución

para difundir una imagen positiva y proyectar el euskera en el exterior hemos adquirido compromisos específicos para favorecer la emancipación de la juventud

consumo responsable deportes solidaridad y voluntariado juvenil el programa que presentamos garantiza la seguridad como servicio público esencial

y vamos a mantener los compromisos de cercanía a la ciudadanía prevención y coordinación información e investigación

ante las nuevas amenazas como terrorismo internacional bandas organizadas delitos monetarios o económicos

para dar respuesta a estos objetivos es fundamental garantizar la renovación generacional y consolidar la plantilla de la ertzaintza

nuestro programa adquiere también un compromiso con la igualdad las políticas públicas tienen como objetivo garantizar la igualdad real

erradicar la violencia de género garantizar la igualdad laboral y salarial favorecer la conciliación y la corresponsabilidad

con la incorporación de medidas para el resarcimiento económico y moral así como el reconocimiento social de las víctimas de la violencia contra las mujeres

como día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

una violencia que nace de la desigualdad existente en nuestra sociedad

la integración social la igualdad y los servicios públicos de calidad euskadi avanza en el ámbito de la reactivación económica y el empleo

los datos de evolución trimestral son positivos y se asienta la creación de empleo el pasado mes de octubre el paro registrado se situó en cuotas de hace cinco años y hemos superado la cifra de las novecientos veinte mil personas cotizando a la seguridad social

euskadi acumula cinco trimestres creciendo por encima del tres por ciento del producto interior bruto es importante

para lograr nuestro objetivo central de la presente legislatura situar el desempleo por debajo del diez por ciento y mejorar las condiciones

para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas activo esencial para dar confianza al entorno económico y favorecer la inversión en euskadi es necesario mejorar nuestra capacidad de inversión especialmente en innovación

ofrecer nuevas oportunidades a la juventud hoy presento los compromisos esenciales del próximo gobierno asentado en un modelo compartido

y a las políticas activas de empleo el primer compromiso es aprobar un nuevo programa marco de empleo y reactivación económica dos mil veinte que dé continuidad a la estrategia conjunta iniciada en septiembre de dos mil trece asumimos nuevos compromisos

apoyo al emprendimiento planes locales y comarcales de empleo formación dual apoyo a las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas

impulso de la inversión en infraestructuras y la movilidad sostenible y desarrollo de euskadi como nodo logístico del eje atlántico europeo

el empleo lo genera la empresa y por eso vamos a primar su competitividad reforzando las actuaciones en inversión innovación internacionalización

es importante trabajar con una visión compartida y una estrategia de futuro euskadi tiene que afrontar

la economía vasca cuenta con una ventaja diferencial en relación a su entorno

el conocimiento y los servicios avanzados así tiene que seguir siendo tal y como hicimos en los años ochenta y noventa con la reestructuración

o en la primera década de este siglo con la internacionalización ahora tenemos que apostar por el conocimiento la innovación y la digitalización

es preciso focalizar nuestro esfuerzo en los sectores y actividades estratégicas con mayores capacidades científicas y tecnológicas con más potencialidad empresarial en euskadi nuestro modelo de crecimiento sostenible se asienta en el plan basque industry cuatro punto cero

promover la especialización y desarrollo de nuevos sectores emergentes vamos a materializar la diversificación científico tecnológica

el hábitat urbano y la construcción sostenible la regeneración de ecosistemas

somos conscientes del papel central de la investigación la innovación y la tecnología por ello hemos comprometido un crecimiento anual

por eso es necesario que todas las empresas vascas especialmente las pequeñas y medianas se sigan incorporando al tren de la innovación que es el tren del futuro el esfuerzo público privado es la garantía para mejorar la competitividad en nuestras empresas y asentar el bienestar social de euskadi

izan duen konfiantza berreskuratzeko el desarrollo de euskadi tiene que ser equilibrado y sostenible

ofrece a euskadi una oportunidad para construir un proyecto de futuro alineado con los desafíos del escenario global de hecho

coincide con el compromiso más firme que como lehendakari he trasladado a la sociedad vasca y que hoy reeditamos nuestro compromiso es

entendemos que los instrumentos de coherencia de políticas públicas nos van a permitir avanzar en las iniciativas orientadas a poner fin a la desigualdad y la pobreza

en este sentido nos encontramos en pleno desarrollo de las nuevas directrices de ordenación territorial una apuesta por la integración de las capitales vascas por el equilibrio

contra el cambio climático la transición energética el transporte público y la conservación del patrimonio natural van a ser el centro de nuestra política medioambiental

comprometemos también una gestión responsable moderna transparente y eficaz euskadi tiene acreditada solvencia

desde la autorresponsabilidad y el cumplimiento de las directrices financieras mantenemos nuestro compromiso con los principios de la nueva gobernanza

evaluación permanente y mejora continua son elementos esenciales del buen gobierno en este sentido hoy comprometemos presentar en los primeros meses del año presupuesto dos mil diecisiete programa de gobierno programa marco de empleo y reactivación económica dos mil veinte y avance del calendario legislativo

en relación al programa de gobierno y los presupuestos dos mil diecisiete somos conscientes de la capacidad económico financiera real

en cualquier caso el programa marco de empleo y reactivación es nuestra prioridad

en cuanto al calendario legislativo partimos de un compromiso

a los cinco pendientes de aprobación en este parlamento se incorporan los catorce proyectos de ley que hemos comprometido en nuestro acuerdo sostenibilidad energética medioambiente cambio climático y conservación de la naturaleza movilidad sostenible

organización y funcionamiento en el sector público vasco transparencia participación ciudadana y buen gobierno ley vasca de educación formación profesional vasca

actualización de la ley del deporte profesiones deportivas ley de víctimas de la violencia contra las mujeres y modificación de la ley de policía vasca

que hoy presentamos a este parlamento nuestro proyecto nace del acuerdo compartimos un diagnóstico y una estrategia

de la sociedad vasca desde el gobierno en este sentido quiero subrayar un acuerdo de gobierno es un acuerdo de país me voy a referir a continuación a los otros dos pilares de nuestro acuerdo

son dos ámbitos de la vida política e institucional fundamentales para el futuro de euskadi

y una sociedad en convivencia el autogobierno como clave de desarrollo político y social de la sociedad vasca todas las instituciones públicas

y la sociedad en su conjunto estamos llamados a participar y contribuir con altura de miras y responsabilidad compartida así lo considero

herri osoaren erronka gisa hartzea proposatzen dut he destacado cuatro cuestiones que van más allá de la acción de una legislatura pacto por la educación reto demográfico apuesta por la innovación y un proyecto compartido de país

pacto por la educación hemos consolidado un servicio universal nuestro reto es la mejora permanente de la calidad de la educación nuestro compromiso es extender la formación profesional dual y aplicarla a la universidad aumentar el carácter internacional de la universidad mejorar la conexión formación empresa fomentar y recuperar el talento apostar por la ciencia la tecnología y el conocimiento dos reto demográfico

hemos analizado las proyecciones de futuro de la población en euskadi y somos conscientes del impacto en el gasto público así

el año dos mil veinticinco el gasto público en políticas afectadas por el envejecimiento de la población ascenderá

la reducción sostenida de la población en edad laboral la caída del número de personas activas y ocupadas

la natalidad y fomentar las políticas de apoyo a las familias el reto demográfico es también el reto de la inmigración la asunción de la diversidad y la cultura de la integración que refuerce la cohesión social

impulsar una autentica convivencia intercultural incluyendo el programa de acogida a personas refugiadas

el rejuvenecimiento de la sociedad vasca demanda también una apuesta decidida por la juventud en el presente

vamos a primar los compromisos para facilitar la integración laboral el acceso a la vivienda y la emancipación de la juventud tres

la innovación social y pública la innovación científica y tecnológica asumimos el reto de la digitalización de la administración el comercio la formación o la sociedad en su conjunto muy especialmente en el ámbito industrial a través del programa basque industry cuatro punto cero cuatro

en cuya construcción participamos a través del proyecto de eurorregión que vamos a fortalecer con la incorporación de la comunidad foral de navarra

que vamos a reforzar y supone la apertura de euskadi al exterior en el ámbito económico y también de las universidades instituciones asociaciones

euskadi que somos y que estamos construyendo la euskadi que queremos proyectar al mundo

cohesionada socialmente abierta al exterior próspera

competitiva inclusiva y solidaria una euskadi con personas formadas y comprometidas con valores en definitiva una euskadi orgullosa de su historia y trayectoria consciente también

y ofrecer en este mundo global abierto y complejo

iniciamos esta legislatura con una razonable expectativa de que se consolide el contexto internacional de reactivación económica y además tenemos el compromiso de dar respuesta a dos pilares fundamentales para nuestro futuro

actualización del autogobierno reflejan una aspiración del conjunto de la sociedad que encuentra su representación

la política tiene una doble componente de competencia y cooperación

y acordamos la grandeza de la política alcanza su mayor despliegue cuando opciones políticas diferentes deciden por altura de miras compromiso de país principio ético o motivo valor superior

y apostar por una causa común es cuando deciden acordar para que gane en la sociedad esto ocurre muy excepcionalmente solo cuando se presentan causas u oportunidades que lo justifican creo firmemente que ahora tenemos ante nosotros dos causas

memoria convivencia y derechos humanos propongo

a ganarnos por mayoría para ganar por acuerdo no conozco causa con mayor justificación ética y política

y asentar una convivencia integradora y con memoria

está inspirado por esta idea en materia de autogobierno propongo que renunciemos a ganarnos unos a otros

un punto de encuentro respetuoso con la pluralidad de sentimientos de pertenencia nacional de nuestra sociedad ninguna solución es mejor que una solución acordada esta es la filosofía que subyace en el proyecto que presento

y al principio democrático capacidad de decidir y obligación de pactar un punto de encuentro para acomodarnos a la realidad plural de nuestra sociedad tenemos la inmensa oportunidad de lograr en esta legislatura dos acuerdos políticos estratégicos e históricos para el futuro de euskadi la clave está en poner en el centro

y en consecuencia obrar de forma honesta y democrática necesitamos altura de miras

para entender que todas las sensibilidades políticas deben encontrar su lugar en nuestro país estamos avanzando de forma acelerada

sin duda hay pasos pendientes el más importante es

el gobierno vasco quiere seguir contribuyendo con la agenda de compromisos con la convivencia y los derechos humanos

compromiso con las víctimas con la memoria con la reorientación de la política penitenciaria compromiso con la cultura

compromiso con los retos emergentes de los derechos humanos y la diversidad creo firmemente que la sociedad los partidos

tenemos el deber la responsabilidad y la capacidad de afrontar una vía para concluir definitivamente de forma ordenada y justa con la violencia y el terrorismo una vía para la convivencia social

euskadi tiene la oportunidad de crecer institucionalmente lo puede hacer desde la experiencia iniciada hace ochenta años y reemprendida hace cuatro décadas

el autogobierno es un elemento fundamental de nuestro proyecto para euskadi

que es necesario el cumplimiento íntegro del estatuto constatamos un fuerte impulso recentralizador y compartimos

precisa de una reformulación asumiendo su propia realidad plurinacional gobierno y parlamento debemos trabajar unidos para defender

y mejorar también la arquitectura institucional que vertebra el país nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo pacto estatutario de futuro

vamos a proponer reactivar la ponencia de autogobierno en este parlamento debe sustanciarse un diálogo abierto entre todos los grupos

de cada formación política tratar de alcanzar un acuerdo plural y con el mayor consenso posible

reafirmo mi convencimiento personal y político es el momento de avanzar en un nuevo marco político de convivencia en euskadi que partiendo del consenso institucional alcanzado en este parlamento articule un nuevo pacto con el estado y sea ratificado por la sociedad vasca

euskadi es una nación que debe ser reconocida euskadi necesita mecanismos de bilateralidad efectiva

reafirmo mi convencimiento personal y político en la cultura del pacto en el principio democrático y el principio de legalidad

este debe seguir siendo el eje de la cultura política de nuestro país así lo creo así intento ejercer mi responsabilidad institucional y así lo haré

euskadi hoy asumo un compromiso nuestra mano está tendida porque es necesario extender al máximo la cultura de la colaboración colaboración entre partidos políticos colaboración entre instituciones

colaboración también con el estado este espíritu de colaboración es imprescindible para alcanzar los objetivos de país que compartimos de cara a dos mil veinte

situar a euskadi entre los tres primeros puestos del mundo en el índice de desarrollo humano reducir en un veinte por ciento la tasa de pobreza reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento consolidar definitivamente la paz y la convivencia acordar

concluyo acudo a este debate de investidura con ilusión renovada consciente de la responsabilidad que asumo como lehendakari si soy elegido vivimos un momento fundamental un tiempo de cambio e incertidumbre

pero es sin duda un tiempo de oportunidad para euskadi sería un honor seguir representando los valores de la sociedad vasca

y trabajo que nos ha permitido avanzar he presentado ante este parlamento el proyecto y los compromisos para este momento económico social

es un proyecto abierto a la colaboración pido la confianza de este parlamento para ser investido lehendakari de euskadi ni he caído

tampoco en ofrecimientos inconsistentes o discursos carentes de una base firme planteo un proyecto sostenible con sensibilidad social y con viabilidad económica para convertirlo en realidad

los principios de realismo y responsabilidad asumo también los principios de solidaridad y justicia social lo he demostrado con hechos

garantizar la viabilidad económico presupuestaria de nuestro proyecto y garantizar la sostenibilidad futura de las iniciativas que pongamos en marcha

aquí contamos con un mayor nivel de confianza social y credibilidad es nuestro capital social en la dialéctica

el buen gobierno los resultados concretos de un servicio público bien gestionado por personas competentes con un comportamiento ético y profesional mi aspiración es que en euskadi seamos capaces de conjugar policy and politics

y la responsabilidad institucional este es mi objetivo ha sido un honor representar a una sociedad que ha trabajado duro la sociedad

sería un honor volver a representar los valores de la sociedad vasca como lehendakari afronto esta nueva etapa con compromiso ilusión y responsabilidad creo en un gobierno abierto al pacto y la colaboración vamos a afrontar una legislatura transcendental para el futuro de euskadi estamos por tanto ante un reto colectivo del que nadie puede quedar al margen

soy consciente de que nadie tiene la razón completa la suma de todas las razones será la que nos permita superar los